arratsalde on desde nuestro grupo como ya han podido ver hemos transaccionado

la iniciativa porque no compartimos la decisión de separar uno de los asuntos públicos en nuestra opinión más importantes como es la política de empleo

a una parte empleo y a la otra trabajo separando de esta manera las políticas relacionadas principalmente con la creación y la búsqueda de empleo por un lado y las políticas relacionadas con el control del cumplimiento de la legislación laboral y de la defensa de los derechos de las y los trabajadores por otro una buena y eficaz política de empleo requiere en nuestra opinión una planificación específica que tiene que partir de un único lugar un único departamento y no puede hacerlo sin incluir materias fundamentales para dicha planificación como son las relaciones laborales o las tareas que desarrolla por ejemplo inspección de trabajo la política de empleo requiere además por su propia importancia

por lo que dicho departamento no debería cargarse con otras responsabilidades como es el caso de justicia y en este sentido era la enmienda que nosotros habíamos realizado la política de empleo debiera ser en nuestra opinión una de las cuestiones más importantes para el gobierno y por lo tanto

de la manera más integral posible entendemos que esto no va a ser posible o cuanto menos va a tener un grado de dificultad mucho mayor con el actual diseño en dos departamentos

necesitamos trabajar para vivir y nuestras vidas están fuertemente condicionadas por las condiciones y características de nuestros empleos el empleo es parte central en nuestra vida el empleo y las características y condiciones del mismo y por eso

no les cuento nada que no sepan así lo demuestran de hecho todas las encuestas y estudios

y en los que de manera continuada la principal preocupación de la ciudadanía entre las muchas cuestiones por las que se les pregunta es precisamente el empleo o mejor dicho la falta del mismo el desempleo los distintos indicadores coinciden en que el desempleo y la precarización de las condiciones de trabajo están entre las principales preocupaciones de las personas que componemos la sociedad vasca

lo necesitamos para vivir y lo necesitamos sin condiciones precarias para poder vivir con un mínimo de dignidad y la realidad hoy en euskadi es que el desempleo se sitúa en torno a las ciento cuarenta mil personas

es verdad también que somos una comunidad que tiene menos tasa de desempleo que otras del estado pero también es verdad que el noventa y tres por ciento de los contratos que se firman son temporales a pesar de que supuestamente las últimas reformas laborales iban a acabar con la dualidad entre trabajos fijos y temporales o así al menos nos lo intentaron vender el empleo creado es además de muy mala calidad precario y de corta duración junto al desempleo y la temporalidad tenemos un mercado laboral donde se dan abundantes abusos contra las y los trabajadores abusos que han de ser combatidos desde la política de empleo de manera integral

porque tienen que ver mucho con la cultura empresarial y de trabajo y no podemos tratarlo solo desde el punto de vista de la fiscalización que además en la mayoría de los casos se produce a posteriori también en esta materia como en otras entendemos que la prevención es fundamental entre otras cosas porque cuando llegamos tarde en materia de condiciones de trabajo la consecuencia última

de las personas trabajadoras anteayer conocimos los datos de aumento

durante el año pasado las características del empleo como las que he mencionado y otras temporalidad precariedad abusos horas extras ilegales etcétera

en el departamento ahora mismo de trabajo y justicia sino también a las políticas activas de empleo que se encuadran en cambio en el departamento de empleo y políticas sociales

son dos cuestiones que para nosotros además de ser objetivos políticos fundamentales están íntimamente relacionados entre sí

es que el gobierno las englobe en un mismo departamento para ser más eficaz por lo tanto si compartimos y creo que así es y así se ha expresado también en esta cámara que la política de empleo debe ser una cuestión fundamental para la acción del gobierno no podemos de ninguna manera trocearla para repartirla en diferentes departamentos nos parece un error tremendo que puede tener consecuencias negativas directas para la mayoría social trabajadora del país tenemos muy presente además en una materia como esta la opinión de los sindicatos que ya han expresado su rechazo y pegas a esta decisión en opinión

y solo se justifica por la necesidad de crear más departamentos para dar acceso en el ejecutivo a un nuevo socio de gobierno y en opinión de comisiones obreras es una decisión que no se entiende muy bien puesto que las políticas relacionadas con el empleo tienen que estar integradas y porque además esta decisión podría dejar arrinconado el marco de diálogo social en un pequeño área de gobierno un área de gobierno además que nuestra opinión

esta decisión puede complicar además la interlocución con las centrales sindicales las cuales van a tener que hablar con dos departamentos sobre cuestiones

esto desde luego a nosotras nos parece ser menos eficientes y seguramente aumentará la burocracia en el desarrollo de la gestión de las políticas de empleo no tenemos claros en definitiva cuáles son los argumentos para que las políticas relacionadas con el empleo se separen en dos departamentos

no vemos por ningún lado las ventajas al contrario solo vemos desventajas en esta decisión que nos pilló por sorpresa y sobre la que créanme hemos reflexionado por si encontrábamos las ventajas del actual situación de división en dos departamentos de las

responsabilidades relacionadas con la política de empleo no las hemos encontrado no nos queda más remedio que concluir que la única razón para este diseño no ha sido otra que la de encajar el puzzle de reparto de tareas de gobierno entre los dos partidos que sustentan el gobierno

que crean conveniente en las tareas de gobierno pero no a costa de dividir y separar una materia tan fundamental y tan sensible para la vida de las trabajadoras

garantizar que el empleo tanto el existente como el que se genera sea un empleo de calidad con condiciones dignas sin riesgo para la salud salarios en condiciones etcétera

es necesario unificar en nuestra opinión en un mismo departamento lo que se ha separado en empleo y trabajo una buena política de empleo creemos que no es solo consigue o la que pretende bajar la tasa de desempleo por debajo de un décimo por ciento sea el que sea sino que es aquella

en condiciones y que por lo tanto considera el control y vigilancia del cumplimiento de la legislación laboral como parte de empleo y no como algo ajeno a la misma y que por lo tanto pueda situarse en otro departamento con otras materias como en este caso es la de justicia nuestro grupo político votará por lo tanto a favor de esta transacción y además nos consta

con los responsables de los diferentes grupos que hay o debiera haber mayoría suficiente en esta cámara que comparte esta opinión yo no sé todavía

si esto se va a reflejar en el sentido del voto me gustaría que sí y por eso pido con honestidad

que consideren que estas materias estarían mejor

que voten a favor aun sabiendo que al gobierno esto le puede generar un problema pero yo estoy seguro que aunque la iniciativa saliera adelante serían ustedes capaces

señoras consejeras señores y señoras parlamentarios buenas tardes a todos

de que usted ya ha hablado en otras ocasiones que es la creación de empleo de un empleo digno de calidad de un empleo estable para las decenas de miles

ciudadanos de esta comunidad autónoma que quieren trabajar y que no lo pueden conseguir y respetamos no puede ser de otra manera también cuáles son las potestades que establece la ley de gobierno y que quedan en su mano que es precisamente la creación y la extinción de los departamentos o la modificación o la distribución de las competencias entre uno departamento pero entendemos que es labor de esta cámara precisamente la labor de control al gobierno y en esa labor de control al gobierno nos permitimos aconsejarle

más pensando en un gobierno de pacto entre dos partidos es muy complicado hacer una coalición

en una única dirección pero lo que tiene que hacer usted es pensar en los ciudadanos y los ciudadanos tienen como principal preocupación en este momento precisamente la creación de empleo y de un empleo

nos ha repartido una competencia fundamental como son las políticas de empleo en dos departamentos lo podría haber hecho con otros podría haber cogido el departamento del señor darpón y haber hecho uno de salud y otro de sanidad y que fueran miembros de distintos partidos los que

de esos departamentos diferentes consejeros o el de comercio y turismo pues hacer uno de compras y otro de viajes pero es que en políticas de empleo en empleo trabajo nos parece muy delicado que existan dos criterios diferentes de las dos consejeras de las que dependen estos departamentos

en direcciones diferentes y esta mañana hemos tenido un ejemplo muy claro de ello cuando se ha debatido de lanbide cuando hemos hablado aquí

de este fundamental instrumento para la creación de empleo

una opinión y el portavoz del partido socialista tenía otra las críticas hacía el estado actual de lanbide el diagnóstico que se hacía era diferente

preocupa y creo que a los anteriores portavoces que han intervenido en este asunto también les preocupa y preocupa a la mayoría de esta cámara que tengamos políticas diferentes

por este tema pero sí me preocupa considerablemente que en un futuro las decisiones que se vayan a tomar no sean en una misma dirección como hemos visto le digo en el ejemplo de esta mañana y a la hora de repartir los presupuestos para poder tener instrumentos para realizar las políticas que las consejeras consideren pues al final habrá uno que tenga presupuesto y el otro que no lo tenga y eso creará disfunciones incluso entre los propios altos funcionarios del gobierno vasco a la hora de seguir las instrucciones

a políticas o soluciones complicadas yo entiendo que usted no haya querido deshacerse

todas las políticas de empleo y la creación de empleo porque ya hemos visto cuales suelen ser las soluciones cuando el partido socialista se hace cargo de esto y esto lo hemos vivido y los índices están encima de la mesa

y vemos que el crecimiento es positivo pero que tendría que ser

ustedes más ambiciosos y para ello pienso que precisamente la decisión que ha tomado de repartir estas competencias las relaciones laborales y la seguridad social por un lado y el resto de las políticas y lanbide por otro

no es la correcta y por eso dentro del respeto de lo que son sus propias competencias que así lo establece la ley de gobierno nosotros

en esa labor de control le instamos a que precisamente modifique ese decreto de estructura lo cambie y vuelva a unir todo lo que son las políticas

en un único departamento para conseguir los objetivos que desde el primer día usted puso encima de la mesa que son la creación de ese empleo
estable y de calidad muchas gracias eskerrik asko ruiz de arbulo jauna

muchas gracias presidenta hoy debatimos la iniciativa del grupo

departamento mi grupo parlamentario los socialistas vascos

y decidimos no presentar enmienda porque considerábamos que no era ni discutible la cuestión es muy clara y viene regulada claramente dentro del articulo ocho de la ley de treinta de junio de mil novecientos ochenta y uno la ley de gobierno y conforme es al lehendakari como presidente del gobierno al que le corresponde dirigir y coordinar las acciones de gobierno sin perjuicio de competencia y responsabilidades que tengan cada uno de los consejeros

en su apartado b y c que entre las funciones que le corresponden al lehendakari está la de designar y separar consejeros en primer lugar pero también indica claramente

de departamentos siempre que no supongan aumento de gasto público así como cualquier modificación en la denominación o en la distribución de competencias entre los mismos este parlamento aprobó esta ley de gobierno y le dio la competencia

para decidir la distribución de los diferentes departamentos yo no quiero como parlamentaria que el gobierno vasco nos diga al parlamento y tampoco

cada una de esas comisiones cuáles son los órdenes del día porque es competencia exclusiva del parlamento

del lehendakari organizar su gobierno como mejor considere que cumple los objetivos que haya marcado nadie propone un debate aquí para cambiar esta ley lo único que se propone es un debate para un minuto de gloria mediático

velar por los intereses de los trabajadores y en virtud de esa ley se

el decreto de veintiséis de noviembre del dos mil dieciséis de creación de supresión y modificación de los departamentos de la administración de la comunidad autónoma del país vasco para esta legislatura por tanto está tan claro en nuestra normativa que no tiene ningún sentido a nuestro juicio traer hoy a esta cámara la iniciativa planteada por el grupo eh bildu

que es asumible pero que por supuesto absolutamente

pues en un primer momento lo que presentó es una enmienda de adición con lo cual añadiendo un segundo párrafo a lo que había planteado el grupo eh bildu es decir estaba de acuerdo con ese planteamiento y además añadía otro párrafo donde decía

de empleo y trabajo empezaba diciendo centrando así toda su actividad política y técnica del mismo en una cuestión fundamental como es el empleo eso qué quiere decir que solo se centre en empleo y trabajo es decir que quiten también

planteamiento cosa absolutamente absurda porque si hay algo que tiene que estar unido tal cual tenemos nosotros las competencias y las acciones

con políticas sociales porque a través de lanbide todo el ámbito de políticas sociales las políticas de empleo etcétera están íntimamente relacionadas pero luego

que eso estaba mal porque estaba separando políticas sociales y lo que mete luego en la enmienda es que pone sin incluir

en toda esa unión el área correspondiente a justicia

no políticas sociales me he dado cuenta que estaba diciendo que lo quitaran y no

lo que a nosotros nos parece bien es que le corresponde al lehendakari definir que tenía que ir a cada uno de los diferentes departamentos y además es que departamentos perfectamente diferenciables al departamento de trabajo y justicia

muy claras en materia de ejecución de la legislación laboral de las relaciones laborales tramitación de procedimientos sancionadores seguridad y salud laboral a través de osalan la inspección de trabajo la

la atención de las relaciones con el poder judicial la previsión de medios de funcionamiento de la administración de justicia la organización y funcionamiento de los establecimientos penitenciarios la ejecución de las competencias en materia

de impulsar el diálogo social de atender a la negociación colectiva siendo también

y en los que creemos para acordar políticas que mejoren la calidad en el empleo y las condiciones laborales

en la lucha contra el fraude laboral labores como la inspección de trabajo y la seguridad y salud laboral y la prevención van a ser ejecutadas de esta forma también con mayor precisión y al departamento de empleo y políticas sociales le corresponden también otras funciones diarias como la política de empleo los servicios sociales la atención integral de personas en situaciones de mayor vulnerabilidad la conciliación de la vida laboral y familiar y la capacidad de inclusión laboral de colectivos con mayores dificultades

y lo referente a la renta de garantía de ingresos que ya también hemos debatido en otro pleno la división entre los dos departamentos de las competencias que antes estaban circunscritas a un solo departamento por tanto no plantea ningún tipo

problema para eso está la función de árbitro del lehendakari y la coordinación entre departamentos que ha sido lo normal y lo habitual que ocurre en cualquier

estatal o de otras comunidades autónomas es que eso está clarísimo y luego dentro del acuerdo del gobierno entre el pnv y

como primer pilar el empleo como eje básico de la actuación política del conjunto

no podría ser de otra forma porque la generación del empleo de calidad de todo el gobierno y la determinación al principio de cada legislatura de la distribución de los diferentes departamentos y sus competencias es competencia exclusiva solo del presidente del gobierno en esta comunidad autónoma

a nivel nacional es por ello por lo que mi grupo parlamentario lógicamente

vamos a votar en contra de la enmienda presentada por el grupo eh bildu y de la transacción obviamente

de elkarrekin podemos y espero que el partido popular que en un primer momento lo que hizo fue presentar una enmienda que

la iniciativa de hoy y que retiró ayer porque tampoco la veía mucho sentido ahora parece ser que podría replantearse su voto

la frase que ellos habían presentado en su enmienda que nada tiene que ver además con lo que hoy se plantea aquí pero como han metido su frase pues ahora

a favor de la enmienda cosa que no me parece normal porque yo lo puedo entender que esto lo pueden plantear el grupo

un grupo nuevo como el grupo de elkarrekin podemos pero un grupo que ya ha tenido responsabilidades de gobierno que sabe cómo se distribuyen y cada año pueden poner el ministerio de trabajo con empleo con políticas sociales con igualdad quito la igualdad le meto otra cosa y están acostumbrados a ello no entiendo que hoy vengan aquí y me digan no es que como han metido mi frase que nada tenía que ver con lo que aquí se planteaba además

de la iniciativa porque no tiene absolutamente nada que ver y aquí de lo que se trata es de aplicar la normativa vigente

se está discutiendo que se aplica la normativa es lo que se ha hecho por lo tanto

meterse en esa cuestión y por tanto

desde luego es estar a favor porque se cumpla la normativa vigente lo que no entiendo es que aquí se venga o se vote a favor de que aquí no se vaya a cumplir la normativa vigente porque eso yo

pura y clara que dice lo que dice y no hay absolutamente nada más que discutir nada más y muchas gracias eskerrik asko sánchez

erronka el empleo una preocupación una prioridad y un reto compartido volvemos a dedicar un punto en este pleno al empleo aunque sea indirectamente o por decirlo así un poco desenfocado desenfocado diría yo señora kortajarena una

una enmienda del señor hernández y una enmienda del partido popular y ahora un acuerdo de transacción

estas tres aportaciones el señor hernández nos decía que no sabe exactamente los apoyos que va a tener esta cuestión hombre

algunos tampoco tenemos mucha intuición pero parece que sabemos algo más que usted por lo visto

voy a seguir un poco la confección de este texto señora kortajarena no voy a negar sería faltar a la verdad

uno la distribución interna de áreas y funciones del gobierno vasco es una prerrogativa al lehendakari dos la ley que lo establece la ley de gobierno es una norma de funcionamiento básica que es parte fundamental de nuestras

tres si usted quiere plantear cuestiones sobre esto plantee una modificación

siete minutos diecinueve segundos bueno hay otra opción de facto que ustedes ganen unas elecciones y consigan investir una o un lehendakari frente a esta primera tentación

no sé ciertamente si por respetarla en sí esta su iniciativa o por el respeto que profundamente tengo a las funciones de este parlamento

las funciones de impulso y control a la acción de gobierno me parecen esenciales en el ámbito de nuestra convivencia usted

nos trae esta iniciativa en justo derecho yo en representación de mi grupo

usted nos plantea una justificación y dice le cito el nuevo gobierno nos ha anunciado que el empleo es su principal prioridad social

es tener más empleo y de mejor calidad el nuevo gobierno ha asumido el compromiso de reformar y modernizar lanbide gobierno gobierno pero esto dice usted desafortunadamente no se ha tenido en cuenta en la formación del nuevo gobierno hay dos departamentos diferentes

saca la bola de cristal y dice eso dificultará la gestión y la coordinación y hoy ha puesto un ejemplo se ve que hay muchos y dice

se líe seguramente el que ponía los nombres esto es una descoordinación del gobierno

su solución que es la parte dispositiva de su proposición que se ubique inmediatamente en un único departamento

creo que aquí lo realmente desafortunado es su salto argumental al vacío

un gobierno es una estructura en nuestro caso un gobierno con diferentes departamentos que funcionan sincronizados coordinados

que funcionan sincronizadas coordinadas y así el siguiente nivel un gobierno es una máquina

una máquina que se puede adecuar a los fines a los objetivos que persigue y que como toda máquina lo importante es que actúe con sincronía

y cuál es uno de los objetivos prioritarios de este gobierno el empleo este gobierno ha adecuado su estructura para perseguir más eficazmente ese objetivo

su solución único departamento único proyectando su argumentación

por qué no una única viceconsejería por qué no una única dirección mejor no que nos llevaría a una máquina de una sola pieza

señor hernández usted enmienda

y hoy firma un texto transaccional en la que además de esto hablaba de no más materias que empleo y trabajo

no tengo claro qué está dentro de se han leído el decreto de áreas está perfectamente claro está perfectamente claro esa coordinación está perfectamente claro cómo funcionan esas áreas qué funciones hay

nos plantea una máquina de una sola pieza no sé si será muy eficaz y eficiente señor hernández nos plantea levantar un muro alrededor de esa máquina para aislarla todavía más de otras cuestiones es lo que nos plantea señor

objetivo empleo lo transversal hay unos departamentos en vanguardia empleo trabajo y desarrollo económico son departamentos en vanguardia pero lo transversal está en todos los departamentos otros también perseguirán el empleo

como los equipos en el ámbito deportivo que funcionan unos con más funciones de ataque otros con más funciones de defensa

diseñados para el ámbito del empleo pero por ejemplo aun no estando en vanguardia el departamento de salud

el departamento de salud por poner un ejemplo trabaja en el ámbito del empleo

se creó una dirección de innovación para esta cuestión cuántas empresas se han creado

señor hernández lo transversal si usted sabe mucho de esto lo transversal señor arbulo comparte el objetivo de empleo respeta las potestades de la ley de gobierno pues a usted en este giro casi se le ha roto la cadera

aquí todos pensamos en los ciudadanos y nos da un pequeño detalle

hombre esperábamos un poco más de usted en esta cuestión usted le pedía además al lehendakari en su intervención que reflexione que reflexione le pedía yo le pido a usted que sea usted el que reflexione

sobre las potestades que establece la ley de gobierno

artículo ocho el lehendakari dirige y coordina las acciones del gobierno a define el programa del gobierno b designa a los consejeros y cien crea departamentos o los extingue es decir

qué quién o quiénes cómo el lehendakari diseña la máquina y la mantiene sincronizada coordinada

es ambicioso en materia de empleo el lehendakari ha diseñado una máquina en cuya brújula

señora gloria sánchez señor aiartza tengo claro quién ha ganado las elecciones y quién organiza

y que podemos hacer propuestas y que constantemente las proposiciones no de ley no son más que cosas que se sugieren y se traen a debate a esta cámara

mantenemos nuestra proposición la señora sánchez la verdad es que nos ha mostrado un talante y unas ganas de trabajar conjuntamente

y punto y ya está y además los demás queremos un minuto de gloria pero bueno más allá de eso nos ha leído las funciones que tienen asignados cada uno de los departamentos y nos sugería también el señor aiartza que leyéramos esas funciones bueno pues si entran ustedes en la página de irekia por ejemplo

aparece en ambos departamentos aparece en ambos departamentos con lo cual no sé cómo lo vamos a organizar y usted dice

usted también y la señora gloria sánchez lo mismo porque entender que la coordinación y la colaboración se da así

por sí misma eso también es un deseo es un deseo sí es un deseo porque todos hemos estado

y sabemos que la coordinación es una de las dificultades mayores que suele tener cualquier organización y los gobiernos igual

que tienen posturas muy diferentes por ejemplo en materia de pensiones del sistema propio de pensiones la señora artolazabal en su comparecencia nos explicó que ella defendería un sistema propio de pensiones

era inviable lo comentó así sí

quiero decir que aquí posturas que sean comunes o por sí mismo en dos grupos políticos que son muy diferentes y que tienen

también diferentes pues es posible que se den porque como bien ha dicho no sé si la señora

detrás de todo esto hay personas y por ejemplo la señora san josé

entre otras cosas el tema de no considerar que era alcanzable un sistema propio de pensiones entonces bueno aquí tenemos

pues bueno yo creo que nos deberíamos cuidar un poco de utilizar ese tipo de terminologías señora sánchez teniendo claro que es el gobierno quien lidera

porque si otros temas son muy importantes y son indisolubles si hay consejeras como es la señora arantxa tapia que plantea

debe ser trinkoa y sendoa que necesita tener concentradas todas las materias que están en torno a los temas que ella maneja

como es la creación de empleo y la creación de empleo de calidad

estando lloviendo la que está lloviendo en este momento pues la verdad

para que esté jugándose en una partida de cartas no lo veo yo en este sentido nosotros esperamos que el partido popular se mantenga en su postura favorable a esta propuesta que hemos transaccionado con elkarrekin podemos

que podamos avanzar en este sentido y el gobierno pueda hacer una reflexión

estas consecuencias que plantea esta división son aceptables o no gracias eskerrik asko

el principal argumento que se esgrime por parte del partido socialista y del partido nacionalista vasco pues ha sido

recordarnos cuáles son las competencias del lehendakari a la hora de diseñar el gobierno creo que ninguno de los grupos

hemos discutido esas competencias en ninguna de las intervenciones han ido en ese sentido nosotros hemos dicho que creemos que esa decisión es un error que va a tener consecuencias o que creemos que va a tener consecuencias negativas porque es verdad no tenemos una bola de cristal nadie la tiene pero en esta cámara

vamos a decir en diferentes debates lo que nos parece que va a pasar a futuro cuando defendemos unas u otras opiniones nosotros tampoco tenemos una bola de cristal

consecuencias negativas es verdad que nosotros habíamos planteado una enmienda destinada a concentrar en un único departamento sobre todo empleo

empleo y trabajo no es que no nos hubiéramos dado cuenta el tema de las políticas sociales

están relacionadas con el empleo y otras no pero es verdad que luego cuando se transaccionó pues nosotros

en reconocer eso porque el objetivo era sacar adelante

separar estas materias en dos departamentos a mí

aunque no se ha dirigido expresamente a nosotros sino a la señora kortajarena lo del minuto de gloria porque este tema para mí es un tema muy sensible

pues se juega lo más vital para sus vidas y creo

y menos en esta materia para buscar minutos de gloria el minuto de gloria

por estar aquí todo el día se ha dicho también que no se trata de decir aquí lo que a nosotros nos parece que tiene que ser

no se trata de decir lo que a los grupos parlamentarios nos parece que tiene que ser dónde lo vamos a decir en la calle también por supuesto pero si aquí no podemos dar nuestra opinión política

votamos cada cuatro años elegimos directamente un gobierno que haga lo que le parezca y ya está y además pues un final en el que han dicho no hay nada más que discutir

lo discutimos no planteamos levantar ningún muro

tener en un departamento esas políticas no planteamos luego levantar ningún muro alrededor de ello para

de hecho el empleo es una cuestión que también tiene que ser transversal al resto de departamentos nosotros lo que hemos dicho en mi intervención o al menos lo que he intentado expresar

de una política planificada de empleo que salga desde un único sitio eso es lo que he dicho yo no propongo levantar ningún muro

que todos los departamentos que decidimos o en este caso que decide el lehendakari

levantar ningún muro aunque reconozco que la expresión le ha quedado muy bonita y

es que es competencia del lehendakari diseñar el gobierno nosotros no hemos discutido en ningún momento esa competencia nosotros lo que décimos y yo

lo que décimos es que con esta enmienda las políticas relacionadas con el empleo que es una cuestión fundamental se van a desarrollar

al salir de un único departamento eskerrik asko eskerrik asko hernandez jauna

pero parece que en sentido contrario de lo que intentaba me ha convencido para votar a favor de la iniciativa

norma pura y clara yo lo de pura la verdad es que no lo comparto no es que piense que la ley es impura es que no sé

pero clara lo es y mucho y ese artículo ocho dice que efectivamente en el apartado c el lehendakari tiene la potestad de hacer un decreto con la estructura de gobierno pero no dice un solo decreto

del dos mil dieciséis con el que crea la estructura y las competencias del gobierno actual pero como no dice solo un decreto nosotros desde aquí lo que hacemos es pedirle instarle

eso sí o sugerirle que haga un cambio y que adecue esa maquina que ha dicho el portavoz de partido nacionalista vasco que es el gobierno que va a cumplir una serie de objetivos

y no pasa nada por hacer un nuevo decreto de gobierno y determinadas competencias

las pase al departamento donde consideramos nosotros que deben estar que es junto con

modifique el decreto del gobierno y traslade esas competencias que ahora están en el departamento de trabajo y justicia que se quede como justicia

políticas sociales y juventud ese simple cambio le pedimos y creo señora sánchez que este sí es una materia o es objeto de debates dentro de esta cámara que usted ha denominado de debates estériles yo creo que no son estériles todo dependerá del señor lehendakari

nunca es estéril siempre es positivo y más en materias y asuntos que sí son competencia de esta cámara porque usted dice que como eso es una competencia exclusiva del lehendakari los demás no tenemos derecho a opinar me resulta curioso que lo diga usted si mirábamos hoy el orden del día del pleno

hablaba de la central nuclear de garoña hablaba de las competencias del consejo de seguridad nuclear que desde luego no son competencia de esta cámara en cuántas ocasiones en esta cámara en mi corta experiencia como parlamentario hemos debatido

sobre asuntos que no son en absoluto competencias ni de esta cámara ni del gobierno al que nosotros apoyamos o controlamos eso es lo más habitual

de los intereses de los ciudadanos y de esos intereses es de los que nos tenemos que preocupar nosotros y vuelvo a insistir para cerrar mi argumento el gobierno tiene que ser no un gobierno

sino un gobierno dirigido a los intereses de los ciudadanos y para evitar problemas

tan sensibles tan delicados y que nos preocupan tanto a todos como ha quedado claro esta tarde lo único que le pedimos es que modifique dentro del ejercicio sus potestades ese

bueno la señora kortajarena ha señalado

ella quería sugerir unas opiniones y evidentemente debatir opiniones se pueden debatir

no pasa de poder ser una opinión aquí como es este caso nosotros podemos opinar o los distintos grupos políticos pueden opinar de una forma o de otra

de la ley de gobierno es clara es al lehendakari con independencia de las opiniones de los diferentes grupos políticos

cómo considera que es la mejor distribución entre los distintos departamentos y es lo que ha hecho evidentemente

en su enmienda transaccional ustedes no están sugiriendo ustedes están queriendo imponer al gobierno una opinión de los otros grupos parlamentarios de esta cámara porque dicen

inmediatamente en un único departamento todas las responsabilidades correspondientes

eso es yo tengo una opinión distinta y quiero imponerle al lehendakari mi opinión y eso no puede ser así porque hay una ley que dice muy claramente que no le corresponde a este parlamento y en este parlamento nosotros aprobamos esa ley y mientras no se modifique esa ley que no se trata de eso

al que le corresponde decidir cómo considera que tiene que distribuir los departamentos para conseguir precisamente lo que se quiere conseguir que es mejorar en el empleo y en la calidad del empleo

yo en mi primera intervención está muy claro en el acuerdo de gobierno firmado por el partido nacionalista vasco y por el partido socialista de euskadi que eso

en las materias que le correspondan con el empleo y eso no va a impedir a que cada uno tenga que hacer lo que tiene que hacer con las competencias y las atribuciones designadas y al grupo elkarrekin podemos al señor hernández le tengo que indicar que evidentemente bueno ustedes están en la misma línea que el planteamiento que han presentado en este pleno el grupo eh bildu han hecho ahí el giro como he indicado primero decían que quiten política sociales ahora no hacen referencia a eso

pero es que aquí no se trata de decir lo que nosotros consideramos y para intentar imponérselo al gobierno es que eso es algo que le corresponde

que en nuestra comunidad autónoma es el lehendakari como exactamente hace lo mismo

qué departamentos va a realizar y cómo cambia las diferentes competencias y atribuciones entre los distintos departamentos porque no hay una legislatura

estamos acostumbrados a ver cómo cambian y cómo cambian las áreas y pueden ir juntándose

otros y señor ruiz de arbulo es que sigo sin entender

esta iniciativa usted tenía muy claro porque hemos hablado que era competencia clara del lehendakari la distribución entre departamentos

veo que su iniciativa no tenía nada que ver con la materia en cuestión la retiraron ayer

en contra de su voluntad se la han metido para forzarle a que vote a favor de la iniciativa de eh bildu y de podemos

como ha metido su coletilla que nada tiene que ver con la iniciativa de hoy pues me dice no es que

que votar a favor hombre le vuelvo a repetir ustedes son un partido que están acostumbrados a gobernar que gobiernan en el gobierno de españa que ustedes están acostumbrados a hacer eso entre los ministerios continuamente

que un gobierno que tiene responsabilidades de gobierno puede

que va a votar simplemente porque le ha metido esa frasecilla que nada tiene que ver y se ve obligado por eso yo creo que con independencia que hayan metido o no esa frase

o lo que ustedes planteaban al principio que nada tiene que ver ustedes son libres para

y al menos se abstengan aunque no voten en contra para que una iniciativa que

debatirla es decir podemos debatirla pero no le corresponde al parlamento decidir

los departamentos pueda salir aprobada aquí porque no tiene ningún sentido y además

es muy claro en ese sentido amaitzen joan así que les invito a que se lo piensen todavía que todavía

muy brevemente señora kortajarena que yo sepa he respetado su función de impulso en todo momento la he respetado y lo de absurda he visto mis notas

coordinación nos dice usted la coordinación es un deseo puede ser un deseo en la acción de gobierno

es una cuestión que a día de hoy por lo menos que sepamos usted y ningún otro de los firmantes posibles apoyos que tenga esa iniciativa aquí han traído ni han probado

yo lo que les he planteado es una reflexión bueno no sé lea lo que ha planteado

le dice al gobierno le dice al lehendakari que ubique inmediatamente

señor hernández dice que el principal argumento que hemos utilizado y yo hablo por mí

es el de la ley el argumento legal el argumento de las competencias bueno si lo tenemos que cuantificar de alguna manera a esa cuestión le he dedicado tres minutos

que es este gobierno o sea por lo menos atendiendo a esa cuantificación

no es mi principal argumento por diseño tampoco es mi principal argumento

y yo le he hablado también desde lo transversal desde lo transversal al objetivo a uno de los objetivos prioritarios de este gobierno el empleo

transversalidad señor arbulo he visto que reflexiona rápidamente usted ha reflexionado entre una intervención y la otra y ya tiene claro el sentido del voto reflexiona muy rápido

que el lehendakari le escuche estoy seguro que el lehendakari le está escuchando estoy segurísimo que el lehendakari le está escuchando y le sugiere que ajuste una máquina

nos dice esto porque todas las máquinas necesitan un ajuste y yo le pregunto

cuándo se ajustan las máquinas señor arbulo

cuando no funcionan cuando no funcionan con sincronía ahí se ajustan las máquinas

es un planteamiento transversal que tiene ese objetivo y esta máquina funciona y va a seguir funcionando sin más

persiguiendo unos objetivos prioritarios entre ellos como prioridad principal el empleo

según las estadísticas sanitarias al menos dos personas de las que hoy nos sentamos en este salón corremos el riesgo de sufrir un infarto en algún momento de nuestra vida

huelga decir que desde el grupo elkarrekin podemos no deseamos que eso suceda pero si así fuera les invito a que se pongan en el papel de la persona afectada

dispondrán ustedes de dos horas para ser trasladados hasta el centro hospitalario más cercano o en su defecto para recibir la atención sanitaria de urgencia que precisen a partir de ese plazo de dos horas

en una situación de angustia vital como esta inmediatamente ustedes o quienes les acompañen en ese trance

al ciento doce y sin duda alguna lo último que querrán ustedes es que el teléfono comunique

reaccione de forma inadecuada ustedes esperan y deben recibir una respuesta profesional resolutiva y sobre todo inmediata

no tiene precio o sí quieren que les diga cuál es ese precio se lo diré el salario medio anual de una persona de las que atienden el servicio de atención telefónica de emergencias ciento doce

euros brutos anuales sí han oído bien quince mil euros plus por antigüedad

el último contrato adjudicado por nuestro gobierno en dos mil once por los socialistas olvidó incluir la cláusula de subrogación del personal lástima de olvido debido a ello algunas trabajadoras han perdido la antigüedad acumulada durante casi veinte años de esfuerzo y sacrificio

siempre y cuando no reciban la baja médica porque en ese caso será aún menor y aún podemos quitarle algún otro concepto por ejemplo tras la adjudicación de dos mil once las trabajadoras también han perdido el plus por transporte que habían conseguido cuando se centró el servicio en txurdinaga

tengan en cuenta que algunas trabajadoras pueden gastar casi doscientos euros mensuales en desplazarse hasta bilbao y sigan sumando o restando mejor dicho

ahora lo cubren entre cinco y nueve trabajadoras casi la mitad con esos recursos el servicio debe atender cada año según la web del departamento de sanidad cuya responsable por cierto se ha ausentado hoy

partiendo de la veracidad de estos datos que no dudamos eso significa que el servicio recibe un promedio de mil doscientos llamadas en un solo turno de trabajo y que cada operadora debe atender

y que debe darle respuesta apropiada antes de recibir la siguiente eso sin tener en cuenta los posibles picos de trabajo que se pudieran ocasionar como consecuencia

en las noches de un fin de semana o como consecuencia de cualquier otro suceso imprevisto pónganse ustedes en su lugar y háganse una idea del estrés y la responsabilidad que eso supone

que si nos referimos al servicio nocturno convendría precisar aquí que el plus de nocturnidad en el ciento doce se paga ahora mismo a uno coma cincuenta y nueve euros la hora

en apuros en la noche de un fin de semana cualquiera un euro y medio la hora el precio de un descafeinado

no es mi intención hacer amarillismo con esta cuestión pero tampoco quiero que ustedes lo tomen como un conflicto laboral más si la situación laboral de esta plantilla es ya de por sí grave

así resulta difícil de comprender que ahora mismo se esté aplicando

a las personas que atienden el teléfono ciento doce la tarea que deben acometer estas profesionales exige conocer lo que ocurre dónde ocurre quién llama y decidir en el plazo de tiempo más breve posible si esa llamada es o no una emergencia y cuáles son los servicios de urgencias que han de ser movilizados para dar la respuesta adecuada quiénes de todos y todas de ustedes se atreverían a tomar esas decisiones en ese tiempo

por qué si estamos hablando de profesionales que reciben una formación específica en la academia de arkaute luego obtienen un salario real que a duras penas supera el salario mínimo

el servicio ciento doce está formado por unas cincuenta personas el noventa por ciento de las cuales son mujeres y no es casualidad que sus condiciones de trabajo sean tan lamentables

siguen yendo de la mano en esta sociedad por muchos discursos buenistas que seguimos escuchando en nuestras instituciones cada ocho de marzo porque cuando estas trabajadoras cansadas ya de padecer esa injusta y sangrante situación

sus demandas fueron ignoradas por nuestro gobierno cuya responsable de seguridad no está aquí presente tampoco hoy y yo me pregunto es este el talante dialogante que va a regir

es este el talante dialogante en cualquier caso que va regir en los próximos cuatros años y conste que aquí no tiene cabida el manido recurso de la estrategia sindical y confrontación

porque hasta hace poco ni siquiera disponían del comité de empresa que les debería garantizar la ley por cierto la ley olvidado la ley esa constitución que garantiza el ejercicio al derecho de huelga pues bien cuando estas trabajadoras han decidido protestar en la calle y organizar paros parciales han sido castigadas con unos servicios mínimos del cien por ciento por parte del departamento de trabajo de nuestro gobierno y yo les pregunto aquí y ahora desde cuándo se aplican servicios mínimos del cien por ciento a personas sometidas a un contrato de telemarketing en qué quedamos

o son esenciales para el país y si son esenciales por qué trabajan para una empresa privada y no forman parte de la administración como el resto de servicios esenciales léase bomberos policías o personal sanitario de urgencias en este punto me gustaría dejar claro que para elkarrekin podemos es importante que el servicio de atención de llamadas de emergencias ciento doce vuelva a ser lo que nunca debió dejar de ser un servicio público atendido por personas con unas condiciones laborales dignas

a quienes se reconozca su especificidad profesional a través de las acreditaciones necesarias para ello y por eso pedimos aquí y ahora que se estudie cuanto menos la viabilidad económica de su publicitación y por si acaso

al contrario la última adjudicación de dos mil once se hizo por un montante

el coste de tener cincuenta personas contratadas con el perfil salarial del personal de atención telefónica de la administración general vasca durante ese plazo de tres años no superaría los cuatro millónes de euros en la primera reunión

la respuesta aún me causa desazón por lo que supone de lógica aplastante recuperar la antigüedad perdida

incrementar de uno coma cinco a dos coma siete euros la hora trabajada en el turno de noche

descansar un día y medio de forma continuada a ser posible hacer coincidir ese descanso con dos fines de semana al mes para poder compartir ese tiempo con sus familias

y a buen seguro entiendo que lo mismo desearían para sí mismas cualquiera de las y los aquí presentes por eso no entiendo que podamos salir hoy

que podamos salir como si el servicio de emergencia ciento doce fuese un servicio telefónico más que podamos salir de aquí sin valorar adecuadamente el esfuerzo diario que hacen estas mujeres

de que el teléfono ciento doce dará sí o sí una respuesta profesional y adecuada día y noche aún a costa de que ellas se dejen la piel por unos míseros mil euros al mes señoras y señores parlamentarios

y por eso mismo sin querer obviar nuestras diferencias políticas desde elkarrekin podemos les pedimos a ustedes que cuando vayan a pedir esta proposición no de ley aprovechen esa oportunidad única

y corresponder así a su generosidad cotidiana con un voto afirmativo que les honre y les ponga a la altura de ejemplo que ellas nos están dando a diario

larrialdiari aurre egiteko egitura osoa la atención a la emergencia requiere un enfoque integral y funciona

siempre por el eslabón o el elemento más débil ese es el motivo por el que en el mundo de la emergencia todos los eslabones o servicios en la cadena han de estar correctamente engrasados y engrasar un servicio es dotarlo de medios humanos y técnicos suficientes

y es dotarlo de condiciones laborales dignas es al fin y al cabo cuidar a la gente que trabaja bajo una gran presión y con un fuerte componente y de entrega sin embargo en estos momentos señores y señoras del gobierno hay sobre todo dos elementos de la atención a la emergencia

uno es la red de transporte sanitario de urgencias del que espero hablar en breve sino se haya una solución en las próximas semanas y la otra pata coja sin duda es el servicio de recepción telefónica de las emergencias o ehun eta hamabi

y por cierto no estaría de más hablando de los problemas de desplazamiento y la perdida de empleo que ya que están aquí las trabajadoras pues habláramos de nuestras dietas de desplazamiento yo siendo alavés cobro trescientos sesenta al mes por venir aquí a trabajar y aquí las persona que viene de gipuzkoa bizkaia andarán en otros números

presidenta y dar la bienvenida a las trabajadoras del servicio que están presentes hoy aquí en esta cámara y darles también las gracias las gracias por el trabajo que realizan todos los días y las gracias por los datos que han aportado

como para la enmienda que presenté en su día y que finalmente ha sido incorporada a esa enmienda de transacción

al señor becerra y al grupo elkarrekin podemos por haber aceptado las aportaciones que hacíamos en nuestra enmienda de totalidad y con otras incorporaciones haber podido llegar a esta enmienda que

desde aquí se lo agradecemos hoy es verdad que se han dado

quizás de temas que pueden salir más en los medios de comunicación pero creo que este debate

o más que los debates que hemos llevado a cabo esta mañana y lo es porque estamos hablando de la situación

y lo es por la importancia del trabajo que realizan porque como se ha señalado el centro de coordinación de emergencias euskadi

recibir todo tipo de llamadas de urgencia y emergencia clasificar la demanda

activar los planes de acción y los recursos y coordinarlos con los servicios pertinentes y todo eso es un lapso de tiempo muy pequeño creo que el debate que hoy vamos a realizar hoy aquí a pesar de que visto que ahora

haciendo aportaciones al gobierno de algo que es de su competencia pero creo que no y además

que se las hagamos nosotros que nos oiga las peticiones de las trabajadoras por lo menos de boca de los grupos que vamos a participar en el debate

a ellas directamente por seguir el orden de la enmienda que hemos firmado y como se ha dicho aquí en primer lugar lo que pedimos es que se dé cumplimiento precisamente a lo dispuesto en el punto veintiséis de esa de gestión de emergencias y por lo tanto solicitamos la inclusión dentro de la estructura organizativa pública también décimos

subcontratado pero eso no es excusa el que esté subcontratado

por las condiciones de trabajo de las personas que desempeñan ese servicio por dos cuestiones una

uno debiera de preocuparse por ellas y dos porque se ocupan de un servicio público

no le quita el carácter de servicio público y por tanto las condiciones de trabajo redundan total y absolutamente en la calidad servicio es cierto como se ha dicho aquí este servicio antes estaba territorializado y hubo un momento que se llevó a cabo un plan de reorganización y modernización y se centralizó todo en un único lugar

en ese momento se presentó aquí una iniciativa por parte del partido nacionalista vasco en el que se pedía nada más y nada menos que en el plazo de dos meses que hoy aquí

se revertiese la situación y se volviese a la situación anterior a que el servicio estuviese descentralizado yo en ese momento dije y lo repito ahora que es cierto que en otros lugares de españa al servicio está

pero también es cierto que yo ya dije en ese momento que había disfunciones en el servicio y que esas disfunciones tenían que ser estudiadas y esas disfunciones que ser resueltas porque utilizando palabras que no dije yo en aquella ocasión pero que las comparto totalmente el servicio ciento doce

un servicio de atención al público en momentos de urgencia en los momentos en los que se presenta una emergencia y si todos los servicios públicos tienen que funcionar bien desde luego este tiene que ser un servicio de la máxima calidad y lo ha sido y lo es y lo es porque cuenta con una plantilla

unas trabajadoras que son capaces de empatizar de dar respuesta humana rápida y eficaz en momentos duros y angustiosos

muchas disfunciones y claro cuando ya el partido nacionalista vasco pasó de la oposición al gobierno no dos meses lleva muchos meses

y de corregir las disfunciones menos porque la situación de las trabajadoras ha ido a peor y eso significa que la calidad del servicio ha ido a peor en primer lugar no voy a explicar las condiciones económicas y de trabajo

el portavoz de elkarrekin podemos pero es que además como también se ha dicho aquí la plantilla es insuficiente y eso hace que en ocasiones llamadas dejen de contestarse en el tiempo en que una llamada de urgencia debiera de ser contestada con lo que supone para quien está llamando que quiere rápida y con lo que supone de angustia a las trabajadoras que saben que no están prestando el servicio que tienen que prestar en el tiempo en el que ellas lo debieran de prestar si la plantilla fuera la suficiente porque es que el número de llamadas ha ido creciendo a lo largo de los años y el número de personas que las

con lo cual blanco y en botella el servicio es peor a esto hay que añadir que es necesario crear una bolsa de trabajo para que se lleven a cabo las sustituciones

porque en este momento las sustituciones las hacen las trabajadoras en muchos casos entre ellas y por tanto tienen que perder horas de su trabajo de sus horas libres de su descanso necesario y si siempre es necesario que los trabajadores cuenten con horas libres en un trabajo como este

la necesidad es aún mayor también solicitamos que en el pliego se contemple la subrogación de los trabajadores y las trabajadoras

no nos olvidemos que se trata de un servicio en el que los conocimientos y la preparación del personal es importante

es que si uno se va al pliego de bases técnicas que han servido para la adjudicación de los diferentes contratos

del personal de la empresa adjudicataria se requiere que además de conocimiento y experiencia en trabajos de atención telefónica y rapidez de escritura sobre el teclado

control emocional y capacidad de control en situaciones de crisis y además se requiere una formación

en el marco legal e institucional vasco en los principales riesgos en tácticas operativas y planes de emergencia en distribución territorial de los medios y recursos disponibles en técnicas de atención telefónica en la utilización de aplicaciones informáticas que dan soporte a las llamadas de urgencia y emergencias en geografía en cartografía

por el sueldo que ganan al mes y esta formación la tienen las trabajadoras que en este momento están prestando el servicio y de hecho

prestando pero en la anterior contratación como se ha dicho aquí

pero su antigüedad es como si hubieran entrado de nuevo

que en la nueva contratación siga la misma plantilla pero conservando sus derechos que se incluya la subrogación y creemos que tenemos medios legales para hacerlo es cuestión de voluntad de voluntad y no de escudarse en que es un servicio subcontratado y solicitamos también que las relaciones laborales de la plantilla se rijan por un convenio adaptado a las particularidades del servicio como se ha dicho aquí el convenio que se le aplican

y creemos sin menospreciar a ningún empleo pero no es lo mismo gestionar una incidencia en el recibo de un teléfono móvil o venderle a uno

un cambio de compañía de telefonía que gestionar una emergencia sanitaria o policial en ocasiones con vidas en juego creemos

sabe que al otro lado no hay una simple teleoperadora lo que hay como digo es una persona con unos conocimientos específicos con unas habilidades

por ello lo que nosotros solicitamos es que esa especificad

a la regularización de las condiciones laborales y creemos también que se desarrolle por medio del gobierno vasco una formación específica que permita el reciclaje

el servicio así como que todos esos conocimientos que poseen sean reconocidos a través de una certificación profesional

que se haga un estudio de viabilidad económica para incorporar al servicio vasco de emergencias

nosotros lo hemos dicho en muchas ocasiones no estamos en contra de la subcontratación nosotros creemos que un servicio público se puede prestar de manera directa

pero también consideramos que determinados servicios públicos y el servicio de emergencias es uno de ellos quizás debiéramos plantearnos y por ello solicitamos

que fuera prestado directamente por la administración nada más muchas gracias eskerrik asko llanos andrea

podría yo también iniciar mi intervención explicando el servicio de emergencias pero como los tres que me han precedido

creo que nos ha quedado claro yo creo que hay que dejar una cosa clara y es que el servicio que se recibe

es un servicio y una respuesta profesional adecuada e inmediata y que eso no lo cuestiona absolutamente nadie

pero claro a mi me resulta un tanto extraña esta propuesta final que la última portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra ha defendido con tanto ardor porque

así como contradictoria entre el punto primero y el segundo les incorporamos pero luego lo estudiamos

nos dedicamos en el cuerpo central de la proposición a hacer desde aquí

no nos gusta y no queremos que se utilice de referencia bueno pero yo creo que no voy a entrar en este momento lo haré después en cuestiones concretas yo creo que debajo de esta propuesta subyacen dos cuestiones que son desde mi punto de vista nucleares

que los contratos públicos no constituyen exclusivamente un medio de obtención de servicios en las condiciones más ventajosas para la administración sino que además a través de la contratación pública los poderes públicos las administraciones pueden realizar una política de intervención en la vida económica social y política que garantice al mismo tiempo un uso eficiente de los recursos públicos pero también la consecución de otros fines de interés público general como pueden ser unas condiciones de trabajo dignas

y debe incorporar cláusulas sociales aún a pesar de que hoy aquí alguien las defienda

allá donde alguien quiere regularlas las recurre y las lleva a los tribunales es una cosa curiosa pero siempre esta contradicción en los discursos a mi me resulta

conmovedora como venía diciendo las cláusulas permiten introducir condiciones especiales en relación con la adjudicación y con la ejecución

garantizar el respeto de los derechos laborales básicos que estén fijados en ese sector la promoción del empleo de personas con dificultades para el acceso al mercado de trabajo

promocionar el empleo de calidad la seguridad la salud laboral la protección del medioambiente los sistemas de protección respetuosos con el entorno

claro que todo esto pueden decirlo las cláusulas sociales y los socialistas creemos y defendemos

que la administración pública debe utilizar estas cláusulas para la contratación para garantizar esos dos efectos que hemos dicho antes y también creemos y defendemos que la administración tiene que tener una actitud

escrupulosamente vigilante para que compruebe que estas condiciones que estas cláusulas que se introducen se cumplen por las empresas a las que se adjudican contratos públicos

fue algo que fue recogido primero por la normativa europea que se ha venido posteriormente no de hace tanto tiempo es bastante reciente ha sido recogido en la normativa de diferentes instituciones la última ha sido la diputación foral de bizkaia que lo anunciaba esta semana y este parlamento

que también lo hizo cuando aprobó la ley tres barra dos mil dieciséis para la inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública algo que no está tan lejos en el tiempo y es por ello por lo que nosotros entendemos los socialistas entendemos que esta es la herramienta de la que este parlamento ha querido dotar a todo el sector público de la comunidad autónoma de euskadi y en la que a nuestro entender debía ser la base sobre la que hubiera descansado la proposición no de ley que se ha presentado

los pliegos de condiciones para la contratación de este servicio de atención de llamadas ciento doce se incluyeran las cláusulas referentes a las condiciones laborales exigibles a la empresa contratista

y en la que expresamente mencionamos que se introduzcan cláusulas de respeto a los derechos laborales que tienen los trabajadores a la subrogación de la plantilla o los planes de formación específicos de forma continua para la mejora del servicio pero no debió resultar interesante la propuesta que realizábamos porque ningún grupo

en un intento de transacción esto debía ser más una cuestión de debate de cara a quien asistía que de poder llegar a posibilitar

deben de realizarlo y no deben de olvidarlo sin exceder de los límites que impone el marco legal vigente

en la negociación colectiva que debe pactar libremente patronal y representantes de los y las trabajadores porque las condiciones laborales se han de regular precisamente dentro de este ámbito de la negociación colectiva aunque también es cierto que hay algunos grupos que han intervenido de forma previa que la negociación colectiva pues tampoco les gusta

y es precisamente esta la segunda cuestión que creo que es nuclear

y es que las políticas de contratación deben de tener como base fundamental el respeto a las condiciones laborales pactadas en base a la negociación colectiva y este respeto es necesario que se incorpore y para nosotros fundamental en los pliegos de la contratación de las licitaciones públicas pero sin que ello suponga

en campos que no son de su competencia porque es dentro del marco de la negociación colectiva donde los representantes de las y los trabajadores legítimamente elegidos por ellos

las condiciones laborales en las que han de desarrollar su trabajo

donde deben de desarrollarse las aspiraciones legítimas de mejora de las condiciones laborales de las y los trabajadores y yo no creo o espero no creer que lo que se pretende por los proponentes de la enmienda transaccional es que este parlamento en este momento suplante a los sindicatos y las patronales en la regulación de condiciones

como no puede ser de otra manera las reivindicaciones de las trabajadoras que están en el servicio de atención de llamadas nos han trasladado porque a mí me parecen muy legítimas

pluses de transporte de retén de domingo de festivos especiales yo

nada pone con respecto a la organización del servicio hablan de que sus condiciones laborales teniendo en cuenta

son insuficientes y quieren mejorarlas y yo creo que están

dentro del marco de negociación colectiva del convenio sectorial que les corresponde que nos gustará o no nos gustará pero es el de contact center

que se aplicará a aquellas empresas que realizan atención telefónica en servicios de emergencia porque la propia clasificación funcional del gestor de operaciones

y también me extraña que algunos hablen porque la subrogación también se recoge en ese convenio colectivo y por eso se podrá poner en los pliegos de condiciones habla del noventa por ciento de la plantilla tendrá que ser subrogada si cambia la contrata y también habla de los dos fines de semana libres al mes

las empresas que reciben contratos públicos pero creemos que son esos los interlocutores los sindicatos y las patronales y no nosotros

las condiciones laborales porque aquí es muy fácil venir pero yo creo que más allá del resultado de esta votación que tal y como va la tarde pues yo me imagino que será un poco parecida a la anterior votación más allá del resultado de esta votación yo creo que lo que tiene que quedarle claro

es que se incluirán por parte del gobierno vasco cláusulas sociales conforme permite la ley con la que le dotó este parlamento hace menos de un año para que se le garanticen sus derechos laborales básicos para que se establezca

se valoren los planes de formación continua por eso aquí no hay que hablar de cuáles son los debates más o menos importantes todos los debates son importantes y este como el que más y por tanto nosotros no rehuimos ningún discurso y damos nuestra opinión e intentamos aportar soluciones porque no es una cuestión de discurso

pero allá donde gobiernan me hacen otra y si alguien ponga usted el ayuntamiento de madrid establece un

en el ayuntamiento le manda el delegado del gobierno que la recurra pues hombre queda un poco contradictorio con la posición que luego tiene el partido popular

proponentes es el tema de la publificación del servicio nosotros hemos dicho que los servicios públicos se pueden prestar de forma directa o indirecta y por eso hay capacidad en la ley para realizarlo y por tanto y por las explicaciones que le he dado y por la falta o nula intención de debate con nosotros no apoyaremos la enmienda transaccional

este parlamento aprobó una proposición de ley para la inclusión de determinadas cláusulas sociales en la contratación pública y tanto nuestro grupo

toda lo referente a la contratación del servicio de atención telefónica

magníficamente y no voy a redundar en ese asunto en ese sentido nuestra enmienda nosotros

que dibuja una trayectoria coherente y que toma como base el principio de legalidad y el principio de realismo

en la enmienda pactada entre el partido popular y podemos la enmienda tiene cuatro puntos pero pongo en duda que el papel lo pueda aguantar todo en primer lugar exigen ustedes que se incorpore el servicio a una estructura organizativa pública como pide

dicho precepto no exige pasar al personal de una empresa privada a una estructura pública no lo exige

y saben por qué simplemente no es factible por muchas razones pero la principal radica en que es imposible publificar un servicio que no

ni siquiera existe una concesión de un servicio público el centro de coordinación de emergencias de euskadi antes centros de coordinación

del ochenta y tres es un servicio adscrito

y meteorología y en consecuencia está dentro de la administración general y de la estructura pública en euskadi

ni se atienden ni se coordinan de forma privada sino pública lo que existe es un contrato de servicios para prestar asistencia exclusivamente en cuanto a la recepción o atención de las llamadas que se reciben en el

pero además el punto veintiséis de la ley que modificaba la gestión de emergencias no dice lo que ustedes dicen que dice

es que el gobierno vasco implementará la estructura organizativa pública de atención de emergencias más adecuada para dar soporte y apoyo

confiere al mismo y al departamento competente en la materia dicho precepto no se refiere a servicio de atención telefónica ciento doce

sino a la coordinación y a la cooperación entre los centros de coordinación de emergencias y los servicios que deben de atenderlas siendo unos como otros

el precepto en su contexto solo cabe ser interpretado en el sentido de que se estudie la fórmula organizativa pública que permita una mayor eficacia

administración general o cualquiera de las múltiples posibilidades que ofrece el ordenamiento en cuanto a procurar una personificación propia a quien gestione los servicios el precepto ni siquiera ni siquiera se decanta

por lo tanto no obliga a lo que pretende la extraña pareja

en el segundo punto exigen que los pliegos de contratación contengan algunas cláusulas que chocan frontalmente con la legislación básica estatal la legislación

de contratos del sector público creen de verdad que quien contrata un servicio mediante un contrato público sujeto a los principios generales de contratación pública

se rija por un convenio específico inexistente que habría que pactar a posteriori en tal caso lo que se les exigiría como coalición contractual

la empresa que resultase adjudicataria se sentara a negociar con los trabajadores y pactase un nuevo convenio cuyas condiciones laborales serían por completo desconocidas creen que necesariamente las condiciones serían más favorables como resultado de dicha negociación creen eso sinceramente

atendiendo a los precios hoy existentes en el mercado qué margen resultaría para la negociación en tal caso existiría el riesgo de que el empresario adjudicatario promoviese en el futuro

cosa cosa que permite la reforma laboral propiciada por el partido popular y que podemos y bildu

tanto los trabajadores como la prestación del servicio y si los trabajadores y el empresario no llegasen a dicho acuerdo de un nuevo convenio

resolución contractual o acaso creen que el gobierno debería sentarse a negociar tales condiciones laborales con los trabajadores de una empresa de servicios

posible pues no el gobierno vasco no va a poder legalmente exigir como condición contractual que el adjudicatario del contrato se siente a negociar

no solo eso sino que lleguen a acuerdos obligarles entre comillas a que lleguen a acuerdos si como

no va a poder resolver el contrato no va a poder resolver el contrato y no lo va a poder hacer señora llanos no lo va a poder hacer porque no lo permite la legislación básica estatal de contratos del sector público y el parlamento no puede obligar al gobierno a que actúe contra la ley

el parlamento no puede obligar al gobierno que actúe contra la ley

por lo tanto dichas propuestas son un brindis al sol un quedar bien

ofreciendo nada más que humo prometer no es proteger los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras es engañarles es estafarles por ignorancia

por otra parte exigen que en el nuevo pliego se aumente la plantilla de dicho servicio

el dimensionamiento actual del servicio es correcto se atienden todas las llamadas y los picos de mayor demanda adecuada y eficientemente y es gracias a la concentración del número de personas que pueden atender llamadas simultaneas en el mismo centro

distinto por saturación como podía suceder antes en algunos casos y la empresa contratada además de la plantilla ordinaria bien dimensionada

cuando exista necesidad siempre a criterio de la administración además la evolución histórica que marcan las estadísticas anuales de llamadas no es la que ustedes han dado

los números son los siguientes y podemos hacer una proyección a que seguirán disminuyendo en un futuro año dos mil doce señora llanos llamadas recibidas un millón

año dos mil trece señora llanos un millón ciento cuarenta y cuatro mil novecientos cuarenta y cinco año dos mil catorce señora llanos un millón catorce mil cuatrocientos cuarenta y nueve año dos mil quince señora llanos

año dos mil dieciséis señora llanos ochocientos setenta y seis mil ochocientos sesenta y cinco eso es un descenso

las estadísticas muestran además que mientras el número global de llamadas

incidentes atendidos eso demuestra que la prestación del servicio es cada vez más eficiente hablan también de desarrollar una formación específica

si se refieren a que se exija un reciclaje o plan de formación continua eso es lógico que lo incluyan en los pliegos y nosotros estamos de acuerdo con esa formulación pero

la capacitación de los trabajadores por los que supuestamente se preocupa

y ello es porque están profesionalmente cualificados para ello y han recibido formación la formación adecuada para ello albergan ustedes alguna duda al respecto creen que el personal al que dicen defender no está capacitado para su trabajo pues bien

ya en contrataciones anteriores y lo será en las próximas es la formación adecuada a las funciones que deben realizar no a las que no deben realizar en el punto tres hablan ustedes que se le reconozca una certificación profesional

son documentos oficiales que expide la administración laboral que acreditan las competencias profesionales que tiene una persona para el desarrollo de una actividad laboral ello hace referencia a las cualificaciones del catálogo nacional

de cualificaciones profesionales por lo tanto no resulta una exigencia que se pueda plantear ni al departamento de seguridad ni a la contratación de este servicio de atención de llamadas existe una cualificación profesional regulada para

en este punto debería ser hablar con el partido popular en madrid hablar con el partido popular en madrid usted es miembro del partido popular señora llanos y plantearlo al gobierno del señor rajoy y el cuarto punto si se me permite señora presidenta el

a la incoherencia es un monumento a la incoherencia porque insta a estudiar la oportunidad y viabilidad económica de incorporar el servicio vasco de emergencias a la estructura de la administración general bien no parece que a su juicio sea preciso estudiar la viabilidad de integrar tal como lo piden en el cuarto punto en el primer punto piden

de esa integración no entiendo absolutamente nada y luego en el segundo punto pues de alguna forma no sé cómo se compagina
que se exija el mismo tiempo por un lado eskerrik asko latxaga jauna

que lo prestan a la pública si las contrataciones a terceros también entran

realmente cuando están hablando de incorporarlos a una estructura pública

bueno en primer lugar quiero pedirles sentidas disculpas a la consejera la hacía en ese asiento bien es cierto que si me alegra verla aquí escuchando

este tema no hubiera llegado aquí y habiendo llegado aquí quiero agradecer en primer lugar el apoyo que hemos tenido

de esta iniciativa por parte de los grupos del partido popular y eh bildu porque cuando hay personas por el medio las diferencias ideológicas deben quedar en un segundo plano

en esta cámara pero en este caso sí lo ha sido y desde luego nuestra intención al presentarlo no era en ningún caso suplantar a los sindicatos como se ha dicho aquí sino traer este tema para que fuera conocido para que fuera público y para que

como digo no teníamos no tenemos ninguna intención de suplantar a los sindicatos y creemos que

no son suficientes para garantizar unas condiciones laborales adecuadas pero

y en el planteamiento que han defendido los dos partidos que soportan al gobierno hay una incoherencia

si este servicio está adscrito al departamento como dice usted señor latxaga entonces sí podemos hablar de las condiciones de trabajo si está adscrito al departamento

y está subcontratado entonces habrá que atender a esas demandas por otra vía y si no se pueden atender esas demandas vía pliego de condiciones

si no se les puede mejorar las condiciones de ninguna manera publifíquese el servicio y lo único que hemos intentado en el último punto es precisamente eso que se valore su posible publificación

es fundamentalmente que este servicio se valore en su justa medida que se valore como una parte más del servicio de emergencias no como una parte aislada de teleoperadoras que no es

y en tercer lugar que se valore su posible publificación si es necesario porque no va a ser gravosa en ese sentido para las arcas públicas

no está cuestionado pero si tampoco está valorado ni económica ni organizativamente entonces

han hablado ustedes del uso eficiente de los recursos el uso eficiente de los recursos se puede atender a través de una posible publificación ya lo hemos dicho

porque usted habla de que el servicio es eficaz señor latxaga y ha dicho cuántas llamadas se atienden pero no ha dicho cuántas no se atienden porque esa estadística la pidieron las trabajadoras y no se les ha dado en ningún caso cuántas llamadas están dejando de atender porque el servicio esté a mitad de personal

lo vamos a preguntar porque no hay una sensación de que haya menos emergencias en el país

las emergencias son las que son y hay que tener personal suficiente y hay que tener el servicio adecuadamente dimensionado y creemos que puede ser que no lo esté ahora mismo y eso es grave y hablando de la valoración que es lo que yo echo en falta

que soportan al gobierno la valoración que se hace de este colectivo ha dicho la señora castelo es que no les gusta el convenio que se les aplica claro es que no son teleoperadoras es que no lo son es que son ni más ni menos que la puerta de entrada al servicio de emergencias de este país

sí hacen un trabajo especializado por el cual no se les está remunerando adecuadamente

es objeto de esta cámara porque lo que estamos hablando es de si las emergencias de este país están adecuadamente atendidas o no y lo secundario es si eso tendrá que ser

en nuestra proposición pretendemos que se aborde eso porque lo que sí tenemos claro como conclusión es que un servicio público mejor no puede darse sin unas condiciones laborales

antzerkia egiten bata bestearen atzetik la parte contratante de la primera parte es igual a la parte contratante

enmiendas que presentan los grupos que apoyan la oposición siempre entran en registro las últimas verdad

de cerrar el debate y no poder contestar señora castelo yo ya estaba acostumbrada a las clases que usted me daba cuando compartíamos juntas generales

probablemente sepa más que yo no le diré que no pero algo sé porque este tema se debatió aquí y fui yo la que debatí ese tema

pero contradictoria con otras que han tenido aquí un raro largo porque si ustedes dicen nos han dicho en el punto anterior que el señor ruiz de arbulo iba a tener pues con el giro una luxación de cadera ustedes se han quedado sin caderas todos todos

su debate de hoy aquí y lo comparase con algunos de los que ha hecho en esta cámara

no ha dicho lo del minuto de gloria cosa que le agradezco pero ha dicho que nuestro debate era para quedar bien con las que estaban las trabajadoras que estaban arriba mire

plantearles cuestiones este debate aquí no hubiera llegado porque este debate lo hemos traído aquí lo ha traído el otro la otra parte del binomio de la extraña pareja

precisamente para plantear un tema porque las trabajadoras no han podido plantear el tema a quien debieran de habérselo planteado yo comprendo que es difícil verdad pasar de la oposición al gobierno del gobierno a la oposición de donde dije diego digo diego

de que si este debate se hubiera traído hace un año ustedes estarían diciendo esto mismo y yo solamente una cosa de verdad señora castelo me quiere usted hacer creer que el trabajo de las persona que reciben la llamada es

que es el mismo trabajo y que las condiciones que tienen que regular ese trabajo tienen que ser las mismas y señor

porque han firmado la enmienda conjunta pero la verdad es que la señora castelo todo lo fía a esta enmienda

ha quedado claro que presenta la enmienda pues para no parecer que el tema no le interesa pero ha pasado

que no hay solución que lo que no entiendo tampoco es es un servicio público usted ha dicho no hay que incluirlo dentro del servicio porque ya es un servicio público eso si

y que la empresa tiene que tener su porcentaje de beneficio

pero también le digo aumentemos la cantidad por la que el servicio sale y en ese caso

y que las trabajadoras tengan unas mejores condiciones laborales es tan fácil como eso pero además le voy a decir una cosa lo he dicho en muchas ocasiones

yo puedo decir que un servicio no deja de ser público por que se preste de manera indirecta y a través de una empresa pero también

como es un servicio público que el servicio funcione es responsabilidad pública

son las trabajadoras y que las condiciones de trabajo de esas personas influyen en la calidad del servicio y el departamento de seguridad se tiene que implicar en que el servicio funcione correctamente y se tiene que preocupar de esas condiciones y de cómo funciona el servicio usted me dice que las llamadas

porque hay menos plantilla lo que no dice es como se le ha dicho cuáles se quedan sin contestar y yo le diré

eso sí ha aumentado eso sí ha aumentado claro que se quedan llamadas sin contestar porque no hay personal suficiente porque no hay personal suficiente

en qué quedamos en qué quedamos por que ustedes en otras ocasiones vamos la desobediencia al estado es

verdad como no respetan la voluntad de este parlamento hay que ver lo que aquí se aprueba es la voluntad ahora

al gobierno vasco oiga cómo vamos a hacer algo que no nos dejan en el gobierno de españa cosa que no es cierta pero bueno como aquí directamente al gobierno de mariano rajoy no le podían echar la culpa no le podían echar la culpa pues entonces ya

que luego a ver si nos lo van a recurrir mire sabe lo que le digo que en misa y repicando no se puede estar y ustedes dejen

las condiciones de trabajo de las personas que están prestando este servicio porque es un servicio esencial es como usted dice un servicio público y responsabilidad

y que pongan los medios que tienen a su alcance que lo tienen para que este servicio

ya hacía tiempo que no teníamos debate bueno vamos a hacerlo en orden inverso que ya veo que

es que sé que no compartís el temas de cláusulas sociales y que contradicción pura la que has tenido

y la actitud que tenéis allí donde gobernáis y lo que hacéis y le pedís al delegado de gobierno que haga en otros parlamentos en los que

mira que te lo he dicho en el primer turno de intervención para que tú te pudieras defender en ese segundo porque hay gente que en ese primero no quiere decir nada jo que no me conteste que yo voy la última no si yo

y lo que defiendo y con ardor pero no me has dado contestación a ello por algo será yo cadera tengo y cintura también para no entrarte en

no incoherente me parece indecente es que se gobierne

y luego venir a un parlamento que no tiene competencias que no es su ámbito de trabajo y que se le pida que regule las condiciones laborales que en otros sitios cercenamos eso es lo que me parece ya no incoherente sino indecente y bueno eso es un poco como venir aquí haciéndose de quijote de los trabajadores verdad a mí ya a estas altura de la película nerea no me engañas nos conocemos de hace tiempo así que menos predicar y más dar trigo donde podéis por cierto con respecto

de bildu que me has dicho que menudo papelón que tiene que hacer la castelo papelón papelón

lo que además creo y con convicción porque te voy a recordar que el tema de desarrollo y las cláusulas sociales en gipuzkoa

porque somos los que creemos que con las cláusulas sociales se puede y no solamente ahí sino también aquí en este parlamento las defendimos

llegar para que no nos la recurran y no las suspendan porque me has dicho más o menos que tengo un papelón

del servicio de transporte cuando gobernaba bildu verdad que recayó en una empresa porque externalizó el servicio bajo su responsabilidad le ganó la adjudicación una empresa de valencia que por cierto aplicaba un convenio

si ejemplos para todos tenemos pero a mí lo que me importa aquí y estoy ya un poco para el proponente que intentó recoger la

me ha dicho que lo traía a esta cámara para que fuera conocido y para que no pase como un conflicto laboral más perfecto pero

un camino o una salida a las trabajadoras y a los problemas que nos han manifestado y por ello en la enmienda que habíamos presentado decíamos

introduzcamos en los nuevos pliegos de condiciones porque estamos en este momento a tiempo porque si hablamos de

pero si estamos hablando de garantizar unas condiciones laborales básicas que

es el convenio que han determinado los representantes de los trabajadores y la patronal del sector nos guste o no nos guste es el marco de referencia que es de obligado cumplimiento para la empresa a partir de ahí cualquier mejora laboral que se quiera plantear que además hay derecho y yo comparto y defiendo que se tiene que realizar en ese ámbito de asociación colectiva para mejorar las condiciones laborales porque usted me decía

claro que sí las de estas trabajadoras y las de otros trabajadores en otros sectores y en otras provincias

no podemos intentar suplantar a la patronal desde los parlamentos que es un poco la tentación que se tiene a veces por determinados grupos y es verdad no son teleoperadoras

son gestoras profesionales de emergencias y así lo tienen por tanto yo creo que aquí lo que nosotros quisimos proponer pero no les pareció nada interesante pero también le he podido decir y garantizar a las trabajadoras que eso se va a incluir en el contrato en los pliegos que va a sacar el gobierno vasco son cláusulas sociales que garanticen los derechos laborales básicos a los que tenéis derechos se recogerá

no me puedo resistir a hacer algunas apreciaciones a tantas cosas que se han dicho hoy aquí

cómo se compagina que se exija al mismo tiempo por un lado incorporar no se sabe si el servicio o las personas que lo prestan a la estructura pública y por otro la persistencia

no me lo puede explicar nadie porque no tiene explicación las llamadas

han bajado el número de llamadas han bajado sabe por qué porque la ciudadanía hace un mejor uso de ese servicio en primer lugar la ciudadanía conoce esos servicios

conoce cómo funcionan y luego también hay otra cuestión que han disminuido drásticamente todas las llamadas huecas las llamadas que no tienen nadie al otro lado las llamadas por broma por error bueno las llamadas de alguna forma maliciosas

si la pretensión de los proponentes es proporcionar a las trabajadoras de la empresa la impresión de que sería factible su incorporación al empleo público ipso facto

saltándose las exigencias de la legislación y los principios de igualdad mérito y capacidad se les está haciendo un flaco favor

algún otro parlamentario así lo ha dicho puesto que no se

en un muro de la realidad en el muro de la realidad existe un contrato de servicios exclusivamente para la atención telefónica de la recepción de las llamadas

no conforma la plantilla del centro de coordinación de emergencias eso lo he explicado antes y creo que usted tiene que saber que en los años noventa lo que de alguna forma hacían ese servicio eran ertzainas propiamente

las condiciones de las personas que tenemos hoy aquí pueden empeorar si debido a esa externalización supuesta externalización

señor becerra convendrá usted que es una ironía del destino que pacten esta enmienda frankenstein con el partido popular exigiendo la inclusión de cláusulas en la contratación administrativa pretendiendo eludir los efectos más perniciosos de la reforma laboral aprobada por el gobierno rajoy y la mayoría absoluta del pp en las cortes generales

independientemente de contenidos la de infringir una derrota parlamentaria al gobierno vasco y a los grupos que lo apoyamos

poco le importan las legítimas aspiraciones de los trabajadores la agenda social sino esa derrota aunque vaya a ver daños colaterales con cara y ojos

y ustedes crean expectativas están creando expectativas que saben que no pueden cumplir lo sabe perfectamente y las víctimas serán desgraciadamente

dice defender la señora llanos también se embarca en esta aventura con un único propósito evidenciar la derrota parlamentaria del gobierno vasco

para saber si era el grupo popular quien la firmaba ustedes le pasan a eh bildu y a podemos por la izquierda quien iba a decirlo verdad el famoso topicazo de que la política hace extraños compañeros de cama

viene al pelo y más visto lo visto esta mañana ustedes señora llanos ustedes prestaron su apoyo a la proposición de ley del siete de abril por ser más posibilista que la ilp original señora llanos

en el debate diciendo nada más y nada menos que lo siguiente

era dejar sin valor la legislación laboral vigente dejar sin valor la reforma laboral saltarse una normativa aprobada por el congreso de los diputados y hacerlo en una cámara este parlamento que carece de competencias para ello fin de la cita hace escasos nueve meses señora llanos menuda coherencia la suya para evidenciar esa derrota se ha liado usted con podemos y eh bildu y no duda en dejar atrás los principios que eran

santo y seña del partido popular cumplimiento de la legalidad vigente la seguridad jurídica incluso el rigor presupuestario la semana pasada su portavoz en la comisión de hacienda el señor ruiz de arbulo decía que si el gobierno vasco presentaba unas cuentas rigurosas

el partido popular estaría ahí para llegar a acuerdos

gestionan así ustedes los servicios públicos allí donde tienen responsabilidades de gobierno creo que no

se debe a una animadversión personal con la consejera de seguridad o para con el propio departamento

desde luego lo que parece claro es que esta distensión

y con este gobierno no está llegando al departamento de seguridad si algún día

espero que no le nombren a usted como interlocutora eskerrik asko eskerrik asko

emilsen manyoma eta joe javier rodallega

eta comisión intereclesial justicia y paz batzordeak

caucako departamentuko hiriburuan manifestó su preocupación por la presencia

donde los paramilitares han tenido el control social económico y político de ese lugar asimismo emilsen y su esposo

derecho en el territorio colectivo de calima igualmente denunciaron las omisiones y tolerancias de la fuerza pública con el tráfico de drogas como miembro de conpaz la lideresa manyoma trabajó

desde mediados del año pasado estaba apoyando la documentación de asesinatos y desapariciones para la comisión

identificando las operaciones de tráfico de drogas y motivando la objeción a las operaciones en su territorio colectivo por todo ello

de emilsen manyoma y de joe javier rodallega bi

este día pretende recordar de forma intensiva e inclusiva a las víctimas del genocidio y exterminio nazi judíos gitanos opositores homosexuales

etcétera entre ellos cientos de vascos y vascas por ello tal día como hoy cabe tener en nuestro recuerdo a todas esos millónes de víctimas

mostrar un frontal rechazo a la negación parcial o total de lo que supuso el genocidio y exterminio como hecho histórico eusko legebiltzarrak